aunque creo que todos nos acordamos de ese momento en que rajoy se lió un poco con el asunto cuando le preguntaron sobre la ciudadanía y cataluña y preguntaba sobre si no perderían la ciudadanía y la europea aquella famosa frase y la europea

de la unión europea tiene la ciudadanía de la unión europea y adquiere en consecuencia una serie de derechos bajo los términos del tratado

dentro de la unión europea que de hecho constituye la piedra angular de la ciudadanía de la unión el derecho de sufragio activo y pasivo

como a las municipales del estado en el que residan en las mismas condiciones que los nacionales de dicho estado y el derecho a acogerse en el territorio de un tercer país estado que no pertenezca a la unión europea

a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier estado miembro en las mismas condiciones que los nacionales de dicho estado también es cierto que posteriormente y en la directiva de dos mil cuatro relativa al derecho de los ciudadanos de la unión

se refunden las diferentes medidas dispersas en otros ámbitos

facilitar el ejercicio del derecho de libre circulación y residencia

reducir a lo estrictamente necesario los trámites administrativos ofrecer una mejor definición del estatuto

la posibilidad de denegar o poner fin a la residencia e introducir el derecho de residencia permanente todos los derechos individuales que dimanan de esta directiva

de la unión en cualquiera de sus estados miembros a diferencia de las regulaciones sobre inmigración no es necesario el consentimiento del estado para que se aplique

eta hori ez da sor daitekeen arazo bakarra el documento para solicitar la residencia permanente consta de ochenta y cinco páginas que incluye un recuento de entradas y salidas

así como presentar múltiples pruebas que demuestren que sí cumplen todos los requisitos de hecho

de las peticiones procesadas por ciudadanos de la unión europea fueron rechazadas o consideradas inválidas por las autoridades

el que ha enviado una carta a todos estos europeos que no completaron bien

indicando que ya no pueden continuar residiendo en el reino unido gure herritarrak ere kezkatuta daude ni erresuma batutik etorri berria naiz

orduan zeintzuk dira gure betebeharrak nuestras obligaciones algunos dirán que no es competencia nuestra pero lo que les pase a nuestros y nuestras ciudadanas nos compete a los que viven en el reino unido en inglaterra escocia gales e irlanda del norte

bermatzea queremos que en función de la evolución de las negociaciones del brexit se promueva la apertura de una delegación de euskadi en el reino unido queremos esa delegación

tanto para recibir sus preguntas y solicitudes como para informarles y asesorarles porque nos preocupan las personas también queremos que haya información actualizada de

al reino unido bien sea por estudios bien sea por trabajo por lo que sea nahi duguna da aldaketa nagusia den honetan gure jarraipena ere

arazoekin pero sí que es verdad que a mí me gustaría

explicar lo que para nosotros y para nosotras es el brexit o puede significar el brexit lo primero que nos gustaría decir con el brexit es que es una decisión del conjunto del pueblo que votó esa decisión que puede ser acertada o puede ser equivocada que puede ir bien

evidente del fracaso de este modelo de construcción europea que está supeditado a los mercados que olvida también a las personas y que olvida la integración

la dimensión que tiene el reino unido y no lo digo por la iniciativa

tan grande económicamente financieramente con esa situación en el mundo no va a hacer que la ruptura sea traumática para los grandes mercados para la macroeconomía y para las grandes empresas no lo va a ser

vasca pero también europea en general de las consecuencias que puede tener

ofreció todas y cada una de las rebajas que pedía el reino unido para quedarse en la unión

económica qué paradoja qué paradoja si lo comparamos con grecia donde la unión

a un pueblo entero y además amenazarle con que si no cumplía las draconianas condiciones económicas y macroeconómicas la iban a expulsar

nos preocupa también por el miedo que se está infundiendo desde los grandes poderes por la tentación que se está teniendo

el problema en que ha sido por consulta popular ese miedo que tienen los grandes poderes a que se consulten las cosas nos parece

del brexit que las masas que las clases populares británicas habían sido manipuladas nos parecen totalmente

por qué no se puede preguntar sobre si estamos o no dentro de la unión europea por qué no se puede preguntar sobre temas económicos por qué no se puede preguntar

es verdad que aquí no hay costumbre pero se puede hacer es evidente que las clases populares europeas están reaccionando ante un modelo de la unión europea unas decisiones que hay dentro de la unión europea están degradando sus condiciones de vida que les deja sin futuro y les deja sin esperanza

es que la mayoría de los países quien está protagonizando esa respuesta esos ataques desde la unión europea es la ultraderecha y cuidado y aquí voy a ser claro quien trate de meter en el mismo saco a quienes rechazan la unión europea

a los mercados solo favorecen uno a la confusión

ultraderecha un debate que hay que hacerlo que hay que hacerlo serenamente y que el brexit puede ser una buena oportunidad para hacerlo y hablar del modelo de la unión europea

de esa salida reaccionaria de ese polo que está naciendo en centroeuropa

de afirmación popular democrática y evidentemente social con los pueblos a la cabeza

está alimentado por determinadas políticas por políticas neoliberales que precarizan

que se ha vivido en la unión europea del trato que se ha hecho a los trabajadores migrantes dentro de la propia unión europea que se han utilizado como carne de cañón también para aprobar medidas regresivas en los países de la pérdida de solidaridad y cohesión territorial y también y sobre todo y últimamente la vergonzosa actuación del conjunto de la unión europea con las guerras de oriente medio y también actitud ante los refugiados abandonar el deber de señalar los responsables de la crisis social y política que vive europa supone abonar aún más el campo de crecimiento de la ultraderecha

proponemos que hace falta un cambio acabando con esas políticas y comenzar otro modelo de construcción europea centrada en los intereses

de los pueblos europeos un modelo cooperativo horizontal solidario y con la voz de los pueblos también del pueblo

insolidaria y una vez que se ha activado el artículo cincuenta del tratado de la unión europea lo que queda es hacer caso por ejemplo hacer caso a las recomendaciones de nuestros conciudadanos y conciudadanas que están en estos

en la que nos está proponiendo cosas que también se han dicho como mantener la libertad de movimiento

de los ciudadanos y ciudadanas comunitarias y de los británicos a trabajar en nuestros países asegurar el acceso a la sanidad a los servicios a las prestaciones sociales y también

cotizados al retorno a los países de origen también es necesario la transparencia

no informe del desarrollo de las mismas y también y a eso sí que le instamos al gobierno del estado a reforzar los sistemas consulares ya que las quejas que están habiendo en el reino

a los miles y miles de ciudadanos y ciudadanas del estado que viven en estos momentos en el reino unido y que están con riesgo de ver vulnerados sus derechos

tiempos y que se ven indefensos también ante la nueva oleada de xenofobia que están viviendo en el reino unido por tanto como decía al principio hemos llegado a un acuerdo

allá hemos aprobado la creación de un foro en euskadi con participación de organismos diversos un foro que se puso ya en marcha que nosotros proponíamos que

pero intentaremos y seguiremos trabajando también desde la comisión de asuntos europeos para estar informados y estar proponiendo temas a ese foro me parece muy importante lo que hemos aprobado sobre la delegación de euskadi en londres sobre

eso sí si el presupuesto lo permite si las condiciones lo dicen nosotros afirmamos que es necesario y así lo vamos a proponer pero nos parece sorprendente o por lo menos concluyente que ayer se abriera la oficina del spri que nos parece bien no lo estamos criticando pero las prioridades ahí se ven estudiaremos

bien atendidas insisto no nos parece mal que se abra la oficina del spri pero si hay presupuesto para eso también lo había para una delegación de euskadi

ahí es donde se ven las prioridades de cada grupo nos parece importante y así también lo hemos propuesto en la comisión de asuntos europeos y exteriores que se vuelva a poner en marcha la comisión bilateral

europeos otra reclamación que hay que hacer y que compartimos y también los sistemas de información que

sitios por tanto desde nuestro grupo trabajaremos desde aquí en acompañar fundamentalmente la ciudadanía vasca que pueda haberse afectado en este caso por el tema del brexit pero no el motivo las causas y las decisiones que provocan causas como las del brexit y no olvidemos

buenas tardes y muchas gracias presidenta bueno yo voy a defender a europa
algunos discursos parece que aprovechan el brexit para subirnos aquí en el marasmo este

no hay alternativa a europa europa es el proyecto más importante que tenemos

por eso el brexit ha sido una mala noticia para todos no hay más que ver pues los medios de comunicación

con lo que hay con las preguntas qué es el brexit hacia dónde vamos qué va a pasar cuáles son los procesos qué pasos vamos a dar pues para ver un poco la preocupación que existe en

en relación con algo que ha sido vuelvo a decir una muy mala noticia para todos nosotros muy mala noticia

todos nosotros para todos los demócratas porque ha sido muy buena noticia para los ultras para los

para los euroescépticos para donald trump etcétera o sea vamos a ver

para estos pues ha sido una mala notica para los demás y es verdad señor martínez tenía usted razón

muy generosa con el reino unido en relación con su planteamiento europa la unión europea las instituciones europeas claro que no querían que saliese el reino unido de su seno de nuestro seno claro que no y ha sido generosa y ha podido poner sobre la mesa cuestiones negociaciones por qué no es que era importante no va a ser grecia el modelo no no va a ser grecia el modelo a seguir es que ha sido clamoroso has puesto sobre la mesa

la balanza el equilibrio el modelo griego y el modelo del reino unido pues no

en relación con cuál era la posición de europa con estas dos realidades políticas pues no no era así efectivamente grecia es muy importante

como una de las peores noticias lo leíamos recientemente una de las personas más importantes de esta última andadura en gran bretaña con responsabilidad política ha dicho que es la peor noticia después de la segunda guerra mundial o sea que

en los medios de comunicación por eso lo más importante en este momento es la prudencia

ayer en el congreso de los diputados pues el presidente del gobierno pues respondía algunos iniciativas de algunos

lo importante es la solidez de la negociación europea en este momento y del acuerdo de retirada

hay que preservar eso sí como elemento fundamental también los derechos de los ciudadanos de la unión que se ven afectados por sus intereses en el reino unido como elemento

una pos negociación una negociación después del acuerdo de retirada y de los acuerdos que tengamos que tomar en relación con esa cuestión para seguir manteniendo las buenas relaciones y para seguir haciendo que todo funcione

que nos afectan a todos y sobre todo por conocer para neutralizar los efectos negativos del brexit contra nuestros intereses y que eso es el elemento fundamental bueno yo cuando

de los tres puntos que tenía los dos primeros era realizar un censo en un listado ficheros de personas es decir claro cuando no está amparado por la ley es una cuestión un poco complicada es decir el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que realice un listado a modo de censo de la ciudadanía del reino unido

efectivamente esos dos primeros puntos de la iniciativa original pues

y lógicamente los ciudadanos de reino unido aquí o los ciudadanos de aquí en el reino unido tienen la posibilidad y eso es lo que hay que facilitar y por eso mismo yo creo que se ha avanzado en la negociación de la iniciativa

y de obtener cómo se preservan esos derechos y cómo se les da información pero en esas dos primeras cuestiones yo creo que ha habido desde luego se han pasado de frenada y se pasaban de frenada afortunadamente se ha modificado y en el tercer punto se hablaba más de la secretaría de acción exterior hay mejor otras fórmulas hay mejor otros organismos en relación con informar a las personas de

o en el país vasco en este caso en relación con sus intereses y con su situación y desde luego que es así nosotros hacíamos un planteamiento de enmienda a la totalidad

los dos elementos fundamentales el primero era instar al gobierno vasco

dirigidas a esos dos colectivos al de los vascos y las vascas que están en el reino unido que tienen intereses en el reino unido ciudadanos del reino unido que están aquí y que tienen sus intereses aquí y que tiene su vida aquí

esas herramientas esos elementos de información de asesoramiento y efectivamente hacerlo por esos cauces que el gobierno puede articular y la segunda

asimismo instábamos al gobierno vasco a que la consultoría especializada eso es lo que salía en la página

con la que opera spri en el reino unido disponga de los medios necesarios para la referida labor de asesoramiento e información para poder proteger los intereses vascos que se puedan ver afectados por el brexit bueno eso que nosotros pedíamos

el gobierno vasco la ha apoyado porque efectivamente ayer mismo han sido rápidos además ayer cinco de abril

ha abierto una oficina y efectivamente es ese cauce de comunicación

materializado por eso mismo hombre a la hora de valorar la enmienda de transacción

porque tenemos una pequeña reserva en relación con uno de los puntos el primer punto de la enmienda de transacción pues habla de que se active un foro con carácter participativo que contenga

efectivamente entiendo yo que ese nuevo foro en el que se integran universidades cámaras de comercio clústeres es

el asunto es entender lo que pasa y dar información a los ciudadanos esperemos que sea ágil porque aunque parece un poco complicado a la hora

estaríamos de acuerdo con el primer punto estaríamos de acuerdo con el tercer punto porque el parlamento vasco

en la comisión bilateral de cooperación en relación con las cuestiones que puedan afectar a la inminente salida del reino unido de la unión europea pues está bien nos parece bien que el gobierno vasco hable con el gobierno de españa con el gobierno central con el ministerio para ver cómo abordan estos temas yo creo que además es lo bueno y yo creo que además

los esfuerzos y la tercera y la cuarta postura

mecanismo similar información relevante o de interés pues bien pues lógicamente formaba parte formaba parte de nuestro planteamiento lo que no estamos tan de acuerdo por eso nos vamos a abstener es con la segunda cuestión

a que en función de la evolución de las negociaciones respecto a la salida del reino unido en la unión europea y en su afección al país vasco siempre y cuando la disponibilidad presupuestaria del momento así lo permita promueva la apertura de una delegación de euskadi en el reino unido vamos a ver ayer ya abrimos y ampliamos

una nueva delegación de euskadi en el reino unido es decir

con un esfuerzo institucional abriendo una delegación es que es un poco contradictorio beneficiar al reino unido desde euskadi abriendo una delegación una delegación es un marco institucional de colaboración de cooperación

nosotros vamos y abrimos una delegación pues es un error es un error yo no voy a votar en contra porque quiero mantener cómo se llama cómo se dice señor prieto el buen rollito en este tema del brexit pero creo que es un error está bien lo técnico

señor arriola está bien que la spri haga pues haga ya sabemos hay empresarios

con prudencia y me ha recordado a cervantes que también decía que la prudencia nunca es miedo y por eso

va a tener más apoyo de los firmantes de lo que significa ayudar y tratar los intereses de los vascos en el reino unido yo sí quería hacer una mirada crítica

y cómo ha llegado esto hasta aquí porque creo que hay conductas y comportamientos políticos

por eso quiero hacer una primera afirmación y es que el brexit es el resultado de un acto de consulta mal utilizado mal enfocado

jugar irresponsablemente con la soberanía y con las consultas para resolver problemas partidarios es altamente peligroso y el brexit es la consecuencia de un juego político irresponsable llevado a cabo por los que dan lecciones de seriedad y rigor

que utilizaron al país para resolver una disputa de liderazgo partidario el brexit también es una parte aunque sea más pequeña

responsabilidad de la propia unión europea porque dejó hacer restó importancia a lo que estaba pasando en el reino unido ha restado importancia a muchos episodios que

importancia a la unión europea en el conjunto de europa y por lo tanto cuando ha querido reaccionar ha sido tarde aunque efectivamente puso muchas cosas

contraria a la permanencia del reino unido en la unión europea

que está generando la actual unión europea es también el resultado de la incapacidad para proporcionar bienestar seguridad en los derechos y también un futuro a la ciudadanía

que no ha hecho nada más que empezar que nadie sabe cómo acabará y que ya cuenta con aliados en otros países para seguir su ruta aunque se hagan desde posiciones ideológicas diferentes

que recorta inversiones públicas que reduce el bienestar de la ciudadanía que no practica la solidaridad suficientemente que permite los paraísos fiscales que no reduce el gran poder para desequilibrar la economía social

pero que tienen mucho poder lejos de generar adhesiones producen rechazos fácilmente manipulables como se ha podido comprobar

son políticas que alimentan desgarros y rupturas los últimos años de la unión europea han sido malos para la política no hubo capacidad para aprobar la constitución europea no la hubo para enfrentarse a la especulación financiera no la hubo para reducir los efectos antisociales

no la hubo todavía no la hay para practicar una política humanitaria con los refugiados tampoco ayuda a los intereses colectivos de la unión europea los continuos

de las diferentes velocidades las que conforman en su seno grupos y subgrupos

y mucha rivalidad entre países y están más cerca del sálvese quien pueda

sus ahora cuatrocientos cincuenta millónes de habitantes y también sus veintisiete países europa tiene que ser más unión de ciudadanos y menos coordinadora de países europa no tiene arreglo acudiendo solo al debate retórico sobre los peligros sobre los populismos tampoco sacando pecho contra los británicos de se van a enterar tenemos un problema y lo tenemos todos lo tenemos los veintiocho aunque nos afecte de manera desigual o aunque tengamos responsabilidades diferentes

y a la pérdida de los derechos de los británicos fuera de sus fronteras europa también lo tiene complicado y además pide reino unido

de indemnización por la desconexión los británicos tienen que rehacer muchas cosas entre otras las leyes que estaban recogidas en la unión europea

sin participación del parlamento y la oposición que plantea lo contrario y que ya ha revocado alguna decisión a través de los tribunales

para la que tan solo tiene un artículo que la regule que es el artículo cincuenta del tratado

de dos mil nueve artículo que obviamente no está preparado para atender este problema la magnitud la envergadura de este problema

a nadie se le ocurrió pensar en que pudiera darse una desconexión como la que estamos viviendo en este momento

afecta a los trabajadores que están allí afecta a los estudiantes universitarios afecta a los derechos de los pensionistas al comercio a la actividad empresarial al turismo

a las inversiones a la seguridad y también aunque afecte a menos personas por lo que estamos viendo últimamente afecta también a la salud mental

o chantajista de algunos cuando invocan a las malvinas o a la europol para hacer sus teorías

evidente que les ha trastornado severamente la unión europea para encarar esta situación necesita a la ciudadanía y para ello también necesita mejorar y disponer de objetivos de más cohesión social y solo así se podrá frenar un sentimiento antieuropeo

que está creciendo la unión europea que a partir de ahora nos va a costar más que nos va a salir más cara porque la vamos a tener que pagar entre menos debe repensar qué puede ofrecer a la ciudadanía para que mejore su aprecio hacia ella la desigualdad estimula el cierre de fronteras

y la exaltación para decidir apasionada y apresuradamente la igualdad abre fronteras derriba barricadas y estimula formas de participación y decisión

la igualdad debiera ser la única bandera de la unión europea es evidente que reino unido no debe salir beneficiado de este portazo que ha dado a la unión europea

que los antieuropeos británicos se vean reforzados en detrimento de los británicos favorables a la unión europea las políticas de fragmentación secesionista

una gran amenaza para la convivencia porque solo comportan rupturas y confusiones

ni el alcance de lo que se decide solo conducen al caos la participación de la ciudadanía en la política cuando se improvisa

de la decisión que se va a tomar cuando no se explicitan las consecuencias

comportan más beneficios sociales ahora se va a empezar a negociar la desconexión para después abordar la nueva relación entre reino unido y la unión y esto va para largo hay dos años de desconexión pero no se sabe cuánto tiempo ni cuánto tiempo durará la negociación para conocer el nuevo estatus de unos y de otros en españa hay trescientos nueve mil británicos residiendo en reino unido hay doscientos mil españoles una parte de ellos

euskadi tiene con reino unido una significativa relación comercial exportamos el sesenta por ciento más de lo que importamos del reino unido tenemos intereses por lo tanto

en este asunto de ahí nuestro posicionamiento a favor de ofrecer atención a todas las personas del país vasco que por residencia estudios trabajo o actividad económica necesitan ayuda para disponer de información y asesoramiento en esta compleja situación

durante bastantes años una atención que busca la coordinación entre gobiernos entre gobierno vasco y gobierno de españa una atención que busca para que no tenga

el señor barrio busca sumar esfuerzos busca ayudar y apoyar busca esa colaboración y esa coordinación y sobre todo busca que los ciudadanos europeos que pertenecen a la comunidad vasca puedan ver protegidos y defendidos sus derechos también por este parlamento y por este gobierno vasco y yo creo que esta es una

absolutamente edificante para este problema que estamos viviendo muchas gracias eskerrik asko prieto jauna

urtean plazaratutako la causa del pueblo vasco azterlanean

en la jerarquización de las entidades colectivas lo que tiende a desaparecer es el organismo intermedio el estado actual que un día será inútil y cobrará vigor el sentimiento patrio de la nación nativa

conciliable con ese estado generalizado que necesita de ella europa

irudikatuko baina recientemente hemos celebrado el sesenta aniversario del tratado de roma un tratado que dio comienzo a una

una época convulsa de guerras entre europeos que se cobraron más de cien millónes de muertos sesenta años de paz que justifican sobradamente el nobel de la paz que se le dio al proyecto en dos mil doce

pero unión no solo significa ausencia de guerras unión europea también significa conquista de derechos que hoy consideramos esenciales

por todo ello resulta traumático ahora que un socio tan importante como el reino unido haya salido del barco

democrático y ejemplar para los demás países del mundo pero el voto de los ciudadanos ha estado condicionado por una campaña favorable al brexit plagada de medias verdades inexactitudes y mentiras

es poco honesto en estos momentos difíciles quiero valorar en primer luga la anticipación que ha mostrado el departamento de desarrollo económico la consejera arantxa tapia tengo entendido que vuelve precisamente hoy de inaugurar ayer

un hito importante en el posicionamiento de euskadi en el nuevo marco de relaciones que servirá como explicaba la consejera ayer de instrumento

tamaño que quieran internacionalizarse introduciéndose en el mercado británico

además podrá acercar a nuestras empresas saber hacer desde ámbitos donde el reino unido es puntero

dos ejemplos un hito este que viene acompañado además del anuncio que proponíamos en el primer punto

las afecciones a personas y colectivos empresariales y que servirá como canal de comunicación entre estos y el gobierno siguiendo el recorrido que marca la transaccional que hemos acordado entre cuatro partidos todos salvo el partido popular

con europa que hace fundamental para que nuestras instituciones obtengan información de primera mano acerca del transcurrir de las negociaciones reino unido unión europea

por último instamos en la transaccional que tiene en sus manos a que el gobierno traslade a la ciudadanía

toda la información práctica que pudiera resultarles de interés a través de irekia en lo que respecta a las medidas que podemos tomar desde nuestro ámbito

aportar las soluciones que proponemos son parecidas dado que las hemos podido recoger una

creo en definitiva que gracias a las aportaciones de los cuatro grupos parlamentarios elkarrekin podemos

partido socialista y nosotros mismos hemos podido llegar a una buena

y felicitarnos por el acuerdo alcanzado y coincidir también con ellos en que aún quedan muchas incógnitas que se deben despejar las negociaciones

de aquí y de allí solamente contestar ahora

acerca de la presencia del parlamento en el foro que

es habitual que el parlamento forme parte de los consejos pero en los foros prácticamente no forma parte ninguno

enteramente a eso tiene usted en esta misma cámara la posibilidad

las conclusiones de dicho foro y al señor barrio la verdad es que yo no le he entendido me gustaría que en el segundo turno me explicara un poquitín mejor

por el tema de la delegación la delegación que se plantea en un futuro siempre dependiendo y condicionado la negociación del reino unido con la unión europea estaría evidente enfocado a dar servicio a los ciudadanos vascos no a los británicos

ese mínimo común denominador entre los cuatro partidos que nos ha permitido alcanzar

que yo creo que por lo menos responde al mínimo exigible y desde luego a poner

tenemos diferencias evidentes porque desde el planteamiento que se hacía de que en un momento dado la unión europea suponga la desaparición de los estados

que desde luego desde euskal herria bildu no solo no compartimos sino que todo lo contrario lo que deseamos es que euskal herria bildu sea un estado y como estado pertenezca precisamente a la unión

unión de estados pero bueno no era el tema tampoco de la moción pero sí por aclarar porque yo creo que el que lo ha entendido perfectamente

la política es porque entendemos que euskal herria es un pueblo tiene aspiraciones como pueblo y lo tratamos como tal por eso efectivamente hablábamos de hacer

que pertenecen a esta comunidad y que están fuera son nuestros ciudadanos

actuar de esa manera efectivamente y además no solo lo entendemos así y

ha soslayado absolutamente hablar de los y las ciudadanas porque ha empezado a hablar desde luego absolutamente todo desde la lejanía queremos que todo funcione en los grandes temas me parece muy interesante

pero no veo lo de los ciudadanos y ciudadanas es lo que nos ha venido a decir

esa coherencia que es por las empresas sí bueno aunque parte de su teoría es que a las y con las empresas no hay que intervenir siempre que se entienda intervenir por pedirles algo por dar

pero no entiende para los ciudadanos tenemos que ayudar a las empresas pero por qué vamos a ayudar a los y a las ciudadanas no defrauda la verdad que eso es para agradecer y cuando hablaba de la prudencia que mostraba rajoy

y desde luego que no vamos a encontrar un punto de acuerdo con ustedes ahí sí que es imposible encontrar ese mínimo común denominador desde luego en este punto

creemos que de la misma manera y lo hemos valorado positivamente

esa asesoramiento a las pymes o a cualquier otra empresa tal y como lo ha dicho

eso es lo que está detrás y sobre todo si es irredundante pues efectivamente no haría falta pero vemos que es un momento donde no es redundante sino que precisamente lo que se nos está planteando

conocemos sino a gente cercana a ciudadanos nuestros que vivan allí y la cuestión es real otra cosa es que en estos momentos no tengamos todavía las claves para apórtales

sobre la relevancia de este tema sí que estamos todos de acuerdo veremos cómo avanzan las circunstancias pero creo que es una cuestión absoluta de acompañamiento en esta situación

sino de cuestiones si se plantean las vueltas derecho además adquiridos que puedan mantenerse aquí y cómo colaborar para que nuestros ciudadanos

señor barrio yo creo que hoy la cosa va de modelos y

para euskadi y para el conjunto del estado y un modelo propio también de proyecto para la unión europea

para las potencias alfombra roja para países con recursos como el reino unido y ahogar exprimir

a un pueblo entero como es el pueblo de grecia y lo ha hecho un gobierno

a grecia y no otro y ese sí que no es nuestro modelo ese modelo de exprimir

ese modelo de chantajear a países no es nuestro modelo porque coincido con las palabras que

ha comentado en el día de hoy aquí me gustaría que fueran las mismas palabras que los dirigentes del partido socialista europeo

dijeran y tomaran esas decisiones en consecuencia de las mismas en la unión europea en la comisión europea ahí donde gobierna junto al partido popular liberales porque además se ha deslizado en algunas de las intervenciones sentimientos antieuropeos de personas que hemos podido hablar aquí nada más lejos de la

europeístas tenemos otro modelo totalmente diferente incluso habría que recoger alguna de las cosas y los elementos positivos que tiene por qué no pero también hay que eliminar otros que no hablábamos de la necesidad de asistir también a los ciudadanos y ciudadanas vascas que están ahí a los ciudadanos y ciudadanas británicas que viven

de funciones que el consulado en londres no está haciendo el trabajo que tendría que hacer y esos son quejas miles de quejas que están recogidas por

granate y esta propuesta que hacemos en esta proposición en este acuerdo que hemos llegado para que euskadi aporte un extra y así se lo exigiremos al gobierno que se ponga en marcha y que ayude pueda ayudar a miles de personas allí

unido a miles de vascos y de vascas que pueden tener como decía la señora larrion vulnerados los derechos adquiridos aquí y también muchos de los adquiridos allí y

con la unión europea porque sinceramente hace mucho que dejó de sonar el himno de la alegría y de significar lo mismo que pudo significar en algún momento hace muchos años con el no a la constitución europea en diversos países que fue ninguneado por

de muchos pueblos hace muchos años que esas melodías de armonía y felicidad

en melodías de políticas de recortes en melodías de políticas de austeridad y en melodías de oprimir y de presión a pueblos como el pueblo en este caso de grecia y otros pueblos como también

para poder hacer política económica fruto de decisiones que se toman en madrid por el partido popular o por el partido socialista en el origen y también por fruto de políticas que se tomaban en bruselas

tenemos otro modelo para la unión europea lo decía un modelo cooperativo un modelo solidario un modelo de los pueblos y un modelo de las clases populares porque pensamos que con esta unión europea lo que ha pasado con el brexit creo que se ha mencionado ahora puede volver a repetirse

en holanda ha habido el brexit tenemos una ola de extrema derecha que está recorriendo la unión europea si pagamos y utilizamos las mismas recetas creo que las respuestas de las clases populares por desgracia van a ser las mismas y también como persona de izquierdas y persona internacionalista

construir una alternativa pero también desde las fuerzas democráticas hace falta que se

a la europa antisocial porque en eso sí que estamos preocupados y si seguimos con este modelo de unión europea las soluciones las respuestas las soluciones

tenemos al frente nacional en nuestra propia casa aquí a escasos kilómetros

a poner nuestro grano de arena también atendiendo a la ciudadanía vasca la ciudadanía británica que vive con nosotros a través de esta proposición no de ley que probablemente
dará lugar a muchas más y a más trabajo en la comisión y este propio pleno para poder seguir trabajando en este sentido eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

gracias presidenta sí brevemente señor martínez con muy buen tono y con esa sonrisa que tiene usted pero su discurso

es apocalíptico la unión europea chantajea

a países pero usted no ve cómo son los acuerdos de la unión europea si generalmente los consejos

es que vamos a ver primero hay que ver un poco y hay que fijarse un poco en cómo es la arquitectura europea en cómo se toman los acuerdos en cómo funcionan en cómo está compuesta la comisión en cómo están compuestas el proceso de decisión es decir es que no se puede decir eso tan alegremente yo quería es un discurso fácil es un discurso así demagógico descalificador

tendrá que decirlo pero su discurso no es europeísta su discurso es apocalíptico la opresión no es verdad efectivamente como en todo lo hemos reconocido aquí como las crisis

es mejorable y hay que afinar y hay que hacer muchas más cosas y efectivamente tenemos que responder a lo que se pretende de la unión europea

le es cómodo hacerlo pero no no creo que sea lo acertado y desde luego a la hora de afrontar el brexit menos porque a la hora de afrontar el brexit si encima hacemos el discurso

es decir es que beneficiamos a esos que les decía yo antes a los euroescépticos a los ultras a trump a los independentistas radicales es que así a esos les beneficiamos o sea que no

discurso básicamente del señor arruabarrena del discurso europeísta

es el proceso integrador el proceso de la unión europea consolidada de la unión política

no me ha entendido lo de la delegación vamos a ver lo de que no estoy de acuerdo yo en una delegación yo estoy de acuerdo en la información y yo sí he hablado de los ciudadanos señora larrion sí he hablado de los ciudadanos y las ciudadanas en la información estoy de acuerdo en que se establezcan cauces y vuelvo a decir

hablábamos de reforzar el papel de las oficinas de la spri y también en hacerlo en la actuación del gobierno vasco estamos interconectados internet funciona se da información

ciudadanas y ciudadanos que están en la unión europea en cualquier momento el gobierno lo puede hacer bueno pues esos son los canales que hay que reforzar

la delegación es un ámbito institucional distinto es decir a usted le dan una patada y generalmente no responde con un abrazo o sea o protesta o denuncia

no quieren tener relaciones con usted en definitiva y usted

eso no tiene nada que ver con dar información a los ciudadanos y los servicios a los ciudadanos y ciudadanas vascas van a estar ahí

de nuestras oficinas comerciales van a estar ahí por parte de nuestros gobiernos del gobierno vasco en relación con la información que se puede obtener y

sobre la mesa nuestra embajada nuestros consulados otra de las apocalipsis del señor martínez del que no funciona nada pues no es verdad eso no es verdad pero bueno a usted esa cantinela de no sé que ha dicho de una organización granate qué ah eso sí

especialista en descalificar las actuaciones del gobierno de españa como tantas otras pero en cualquier caso ahí están

yo creo que pierde un papel como fundamental en un momento de que alguien no nos quiere o alguien quiere desatarse de nosotros y la señora larrion ha vuelto a reivindicar los listados no sé no lo ha hecho

seguida a la hora de buscar la transacción pues desde luego

listados a modo de censo de ciudadanos y ciudadanas que no está regulado por una ley o por una norma no es legal no es legal no es legal o sea que no sé quién le habrá asesorado pero eso lo tiene que usted revisar efectivamente lo de la legalidad es decir de los listados a modo de censo de ciudadanos

eso lo tiene que revisar yo sí he hablado

me ha dicho que no he hablado de los ciudadanos y ciudadanas yo cuando he hablado de la prudencia porque en

a parte de la solidez de la negociación y del acuerdo de retirada he hablado de la prioridad que es preservar los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas de la unión europea con sus intereses en el reino unido

no me ha oído o no me ha querido oír y yo no sé

foralista democristiano europeísta muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

del turno de réplica señor barrio siento expresarme en estos términos pero su argumento contrario a la apertura futura y condicionada de una

residentes en el reino unido me parece inconsistente y sigo sin entenderla después

sigo sin entenderla creo que no que esconde una posición ideológica diferente que no ha desvelado del todo y vuelvo a decir que la apertura de una delegación en londres no supone ningún espaldarazo a ninguna actitud ni estrategia mantenida por el reino unido

al convenio marco de colaboración para la ejecución de proyectos conjuntos con financiación compartida

que pretende firmar nuestro gobierno con las tres diputaciones forales el citado convenio tiene por objeto financiar las actividades del consorcio

así como establecer un procedimiento de contratación respetuoso con la ley de contratos del sector público hasta aquí por supuesto nada que objetar

sin embargo cuando llegamos a la cláusula octava del citado convenio

a la que las partes tengan acceso va a tener un carácter confidencial y que además las partes están obligadas a guardar secreto sobre dicha información

salvo con el previo consentimiento por escrito de las otras partes una cláusula que repito se encuadra en un simple convenio para la cofinanciación de contratos entre las administraciones públicas y que tan solo hace referencia a las fondos públicos que se van a destinar a una programa de ayudas públicas

este exceso de celo y esta prevención a nuestro juicio desmedida no parecen encajar con las buenas intenciones de ser una administración transparente que muestra nuestro gobierno a la menor oportunidad he imprimido aquí una copia de lo que aparece en la página del gobierno sobre transparencia y es muy ilustrativa porque dice

para crear un ambiente de confianza entre el gobierno y la sociedad y de esta manera formar

supone la apertura de todos los asuntos del gobierno para que la ciudadanía información en mano sea capaz de tomar parte con solvencia en las decisiones que le concierne

para que participe y colabore en la construcción de lo público lo de todos

la transparencia dice es una exigencia social que la administración pública debe abordar y cumplir no es una tarea pasiva de dejar ver sino que más bien requiere de políticas que permitan mantener a la ciudadanía bien informada esto es lo que dice el gobierno en su portal de transparencia

es una cuestión tan importante para el desarrollo de este país como para justificar la existencia de este tipo de cláusulas y usarán para su argumentación términos como decisión estratégica mejora de la competitividad en los mercados exteriores sin embargo

en este convenio no estamos hablando sobre cómo orientar la política económica del gobierno sino tan solo de cómo se gestiona el dinero público

dónde y en qué se invierten sus impuestos si un negocio precisa ayuda para implantarse en el extranjero pues habrá que apoyarlo y después será necesario explicar cómo y cuanto se le ha apoyado si no se puede explicar con argumentos comprensibles entonces quizá es que no merecía esa ayuda porque las decisiones estratégicas solo son validas

y entendidas por la ciudadanía y porque si bien entendemos que el gobierno utilice figuras jurídicas de este tipo para facilitar la colaboración entre instituciones

un gobierno al promover negocios y apoyar inversiones tiene deberes y obligaciones

en consecuencia el derecho a la confidencialidad de que gozan las partes contratantes en una legislación comercial está fuera de lugar en estos contratos públicos por eso en nuestro escrito de oposición dejamos claro que una sociedad democrática debe incluir la capacidad de las gobernadas para fiscalizar a sus gobernantes

la ley por eso en elkarrekin podemos no podemos admitir una cláusula de confidencialidad como la establecida en el citado convenio marco el principio de transparencia no es más que la garantía

por lo tanto un convenio marco sin esta cláusula de confidencialidad no debe suponer menoscabo alguno de los intereses del gobierno

ahora bien lo contrario es decir renunciar a la transparencia sí tiene sus riesgos en mi primer discurso en esta cámara dejé claro que en materia de transparencia la credibilidad lo es todo

termino mi intervención leyendo uno de los párrafos de la página web del gobierno titulado para qué la transparencia la transparencia como uno de los pilares del gobierno abierto dice consiste en abrir las puertas y ventanas de la administración para que la ciudadanía recupere la información que es suya y conforme una sociedad responsable

para explicar que podemos se opone al convenio marco de colaboración para ejecutar proyectos conjuntos con financiación compartida

este convenio complementa al del año dos mil catorce firmado por la diputación de bildu en su momento y no sé por qué se ha abstiene bildu hoy pero bueno

en el cual se preveía que cada administración gastaba su dinero y no se juntaba el dinero ni colaboraba ninguna administración había una coordinación

proyectos conjuntos financiados por varias administraciones y lo que se establece es qué porcentaje paga cada administración

porque como todos ustedes saben no tienen un euro y usted nos dice que le preocupa la cláusula de confidencialidad existía la misma

además tiene otra cláusula sobre protección de datos y usted nos dice que quiere saber cómo y dónde se interviene el dinero de todos los vascos en esta materia

a mediados del dos mil dieciséis pidió desde el año dos mil trece

y ustedes tuvieron cumplida respuesta una a una de todas las empresas el proyecto y la cuantía recibida desde el dos mil trece hasta el dos mil quince

y yo lo único que le recomiendo es que hablen con sus grupos junteros y se enteren de lo que plantean

por parte de los socialistas vascos y es que el gobierno vasco aprobó el pasado veintiuno de marzo la suscripción de un convenio de colaboración con las diputaciones forales para establecer esa cofinanciación de proyectos conjuntos en el consorcio vasco de internacionalización que es lo que ha explicado antes el portavoz del partido popular

que fue suscrito el tres de diciembre del dos mil catorce creó aquel consejo vasco de internacionalización con un fin muy preciso y era contar con una estructura integrada

y el objetivo último era incrementar el impacto positivo que la interrelación con los mercados exteriores tiene sobre la competitividad de las empresas de euskadi

propio ni específico y cada una de las partes de ese consorcio seguirá financiando y sufragando las actividades que en materia de internacionalización

establecido a la hora de suscribir aquel convenio

del pasado veintiuno de marzo se autorizó al departamento de desarrollo económico e infraestructuras a suscribir un convenio a esos efectos y en ese convenio se definían aspectos como el régimen de participación financiera de las partes o los proyectos conjuntos el reparto de costes adicionales

vigilancia y control de la correcta ejecución de los compromisos adquiridos y la iniciativa que elkarrekin podemos nos traía esta tarde se opone a la cláusula octava de dicho y los socialistas hemos votado en contra porque hemos considerado que el planteamiento que realizaba el proponente no era el correcto porque se basaba tan solo de forma parcial en una parte de esa cláusula

confidencialidad y no en su totalidad porque el convenio en su cláusula octava tiene un segundo apartado que ha omitido el proponente y era que dice así no obstante las obligaciones de confidencialidad cederán ante cualquier requerimiento administrativo judicial u otro imperativo legal en contrario

sea del dominio público en el caso de que sea conocida con anterioridad al presente convenio en el caso de que haya sido recibida de terceros sin que recaiga sobre ella deber de confidencialidad

haya sido consentida previamente y por escrito por la parte de la que procede la información las obligaciones establecidas en esta cláusula se mantendrán vigentes e incluso con posterioridad

por tanto los socialistas entendemos que el uso de la confidencialidad tal y como está planteada en este convenio marco no provoca dudas ni en cuanto a su coordinación ni ajuste al principio general

impide a los órganos de contratación divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan designados como confidencial especialmente cuando se trate de secretos técnicos comerciales u otros aspectos confidenciales de las ofertas existe doctrina

del tribunal administrativo central de recursos y de origen también comunitario sobre la confidencialidad en la contratación pública por la que se establece los límites de la misma pero también se establece su posibilidad

este convenio marco ha pasado también antes de su trámite parlamentario por el órgano de contratación de euskadi que no ha planteado ninguna objeción respecto a la cláusula ocho de confidencialidad

por lo que entendemos que se dan todas las garantías contractuales para la administración que la legislación establece

de tratar una cláusula en la que se pusiera la confidencialidad nada más y muchas gracias eskerrik asko corcuera andrea

ya a punto de terminar la sesión voy a informar que hemos votado que no

haber votado que no realmente al ver la denuncia del convenio

incluso me pareció que parte del argumento pues podría tener cierta lógica hasta que

del convenio al que se le adjuntaban además los documentos con todos los parabienes de control jurídico económico y normativo del gobierno vasco lo que es no me negará usted ya constituye una garantía en sí mismo

y que lo que busca es una fórmula para la contratación pública conjunta de proyectos de internacionalización donde se reparten a escote los gastos entre las cuatro instituciones

una vez leído el convenio y contrastado con el escrito de usted el señor becerra denunciando que ahí se trataba de una manipulación

del citado convenio en la que se viene a decir que toda la información a la que tengan acceso las partes con ocasión de ejecución de tal convenio tiene carácter confidencial etcétera etcétera pero se salta

que dice no obstante las obligaciones de confidencialidad cederán ante cualquier requerimiento administrativo o judicial

dice que no será confidencial la información que sea de dominio público bien que eso sí que podía haberse denunciado pero más que otra cosa por gastar letras donde no hacía falta

es también uno medio lleno pero una mentira a medias nunca jamás

es decir estamos hablando de un documento y que dice que es confidencial en tanto haya circunstancias para que lo sea por tanto

a esta propuesta pero sobre todo hemos votado que sí a la aceptación del convenio en su actual formato porque la cláusula ocho sobre la confidencialidad entre las partes es una cláusula legal que no entra en absoluto en conflicto con la transparencia debida a los ciudadanos para nada

que define qué cuestiones son de derecho de información de los ciudadanos no se trata de escamotear el conocimiento público de los costos de los contratos que se puedan establecer en el consorcio a quién se contrata y qué se contrata eso se va a saber se va a informar

la confidencialidad de datos de otro carácter que deben preservarse por lo contemplado en la legislación vigente de protección de datos y por reiteradas sentencias por cierto

firmar el convenio con esa cláusula no impide que los contratos se realicen en su desarrollo los cuales están sujetos a la ley de contratos de las administraciones públicas

cuánto en qué y cómo se gasta el dinero público que en definitiva debería ser lo que le preocupe al grupo proponente de la denuncia de este convenio aunque a lo largo del debate he ido confirmando mi intuición de que precisamente

extender un halo de sospecha sobre lo que no debe de generar en absoluto ninguna porque en definitiva lo que se pretende proteger son los datos de los expedientes

y que en ningún caso podrían tener difusión pública si es que por ley tienen carácter reservado que la tienen

en que lo que pretende el grupo parlamentario podemos es decir eliminar la cláusula tampoco otorga derechos donde la legislación ordinaria no los otorga podría denunciarse en cualquier caso le doy una pista

con la séptima y la octava del y con la legislación vigente

pero nunca por limitar derechos más allá de lo que hace la legislación vigente

para terminar denunciar este convenio es como denunciar la carta del día de hoy del restaurante de este parlamento porque tenía secreto en la carta en definitiva

que el convenio continúe su trámite porque su redacción es conforme con la legislación y su redacción no limita los derechos ciudadanos a la información
el secreto de aquí era ibérico de todas maneras muchas gracias eskerrik asko tellería jauna